muy breve con el trámite de hoy cerramos un proceso importante en cuanto a la actualización y conformación de un organismo que está encargado de fiscalizar las actividades económico financieras y contables del sector público vasco

fiscalizadora y por ello tiene que estar garantizada su solvencia objetividad independencia y exactitud principios que se consiguen gracias a la profesionalidad experiencia y conocimientos técnicos de sus miembros y de todas las personas trabajadoras letrados auditores

y por supuesto por los sistemas de trabajo y los procedimientos de aprobación de los informes los socialistas vascos hemos presentado dos candidaturas de reconocida

la ley pero además me gustaría destacar varios aspectos positivos en primer lugar que la elección de las personas que van a conformar el tribunal vasco de cuentas se haga

de las tres quintas partes de los votos favorables de esta cámara en segundo lugar que no solo se ha renovado y mejorado la ley del tribunal vasco de cuentas

de dicho organismo y tercero que contempla la presencia de un número mayor de mujeres tal y como preveía la ley que introducía la necesidad

entendemos que con estas incorporaciones y mejoras contribuimos a generar una mayor credibilidad y prestigio de los órganos fiscalizadores de las cuentas públicas

eta gaur ez dugu errektifikatu behar ratifikatu baizik hoy no rectificamos hoy lo ratificamos ratificamos que el reparto que ustedes han hecho atienda a intereses políticos ustedes convierten el tribunal vasco de cuentas públicas en un instrumento más

consejeros asegurándose así el control de los informes que auditan las principales instituciones vascas gobernadas por ustedes mismos

y es que una cosa son las palabras y los discursos que lo sostienen todo y otra cosa son los hechos la realidad el resultado gaur

no podemos hablar de órgano independiente cargos electos cargos públicos y de confianza en activo pasando de la noche a la mañana a ser los miembros del tribunal de cuentas les aseguro que eso no está dentro de los estándares mínimos de independencia e imparcialidad para este tipo de órganos de fiscalización y esto solo pasa aquí

pero nada ético visto quienes van a ser nombrados ahora se entiende mejor esa negativa esa negativa tajante a establecer un periodo de dos años de carencia

tres personas tres nombramientos que se ajustan escrupulosamente a lo que marca la nueva ley

cumplimiento de la ley con los requisitos exigidos por la ley recientemente modificada por una mayoría amplia de este parlamento sí cumplimiento íntegro como ya he comentado y rigor en el desempeño de sus funciones sí exquisito y riguroso

desde eaj pnv hemos presentado las candidaturas para este organismo en el pasado y en el presente siempre

de la ley y del código ético con el visto bueno de la comisión de incompatibilidades que hoy algunos siguen criticando

a la ley recién reformada aportaciones a la ley ninguna ninguna señor estarrona ninguna pero críticas a los nombramientos

pnv usted habla de dignidad y de que usted

y de la dignidad de este tribunal pues si fuera tan digno no presente candidaturas no presente candidaturas porque hoy

ustedes solo presentan un candidato uno uno y es hombre o sea que por tanto como dice usted del dicho al hecho hay un trecho y si fuera tan digno

ese candidato hombre va a salir gracias a los votos del partido nacionalista vasco y del partido socialista vale por tanto

porque yo creo que ante las críticas que lo único que hacen es

a todas y todos los miembros de este tribunal por su buen hacer por su compromiso con este tribunal por su excelente trabajo en el mismo para garantizar

gracias a él y a todo el equipo que le ha acompañado en estos últimos años porque han dado prestigio y credibilidad al tribunal un excelente nivel para un tribunal

en materia de autogobierno y con esta visión y la relevancia que le damos nosotros a este órgano desde el grupo euzko abertzaleak hemos propuesto como decía antes a tres nuevas personas

todos los requisitos exigidos por la ley recientemente actualizada y reforzada

eusko abertzale taldetik tribu epaitegia ahora lo que nos toca a

el voto de las tres quintas partes de esta cámara por tanto legitimidad toda

también toda cumplirán con sus obligaciones como lo han hecho las personas que ahora dejan sus cargos desde la profesionalidad la honradez

anda apodaca inmaculada cuarenta y seis helguera

maría teresa crespo del campo andrea xabier txokarro amunarriz jauna

totalmente acorde con los retos medioambientales mundiales y sobre todo y ante todo una ley que responde a las necesidades urgentes de nuestro país de nuestras instituciones

de la sociedad vasca es una ley más ambiciosa

a las diferentes administraciones públicas de la comunidad autónoma de euskadi articulando para ello elementos de coordinación entre las instituciones

porque diseña una nueva sistemática para favorecer la relación entre la administración pública y la ciudadanía con el fin de facilitar la participación de esta en la toma de decisiones en materia ambiental regulando el suministro de información

ofrece una gestión más moderna y ágil garantizando el rigor y la exigencia de parámetros medioambientales y simplificando y unificando los procedimientos administrativos pero a la vez manteniendo unos elevados estándares de calidad propios de nuestra comunidad autónoma

en esta nueva ordenación el papel de las entidades locales y las diputaciones forales es el que les corresponde para desarrollar la intervención de los cuatro regímenes en los que se articula esta ley es decir

la autorización ambiental única la licencia de actividad y la comunicación previa cada uno actúa desde sus principios y desde su papel relevante en cada uno de ellos sin prejuicio de que además se emitan informes

de acuerdo con la competencia del órgano ambiental de cada una de los órganos institucionales y también de la comunidad autónoma como principales novedades que incorpora el proyecto de ley cabe mencionar la creación de un consejo

comisión ambiental del país vasco en segundo lugar

para lo cual se elaborará y se publicará con carácter anual un informe de coyuntura

y además se exige la creación de un sistema de información ambiental con acceso público

en tercer lugar un nuevo sistema de intervención administrativa

se crea un nuevo régimen jurídico de intervención ambiental la autorización ambiental única que junto con la autorización ambiental integrada la licencia de actividad clasificada

constituyen el marco de alternativas de autorización ambiental que puede requerir una actividad para ponerse en marcha todo ello en función de su grado de incidencia potencial en el medio ambiente en cuarto lugar la evaluación ambiental donde se promueve la participación del público interesado del público en general en los procedimientos de evaluación ambiental a través del registro de personas interesadas en el procedimiento de evaluación ambiental y donde las declaraciones e informes estratégicos de impacto ambiental emitidos por el órgano ambiental

vinculantes en euskadi en lugar de ser determinantes tal y como establece la normativa básica estatal en euskadi vinculantes

ambiental el fomento de la participación en el sistema

o la compra y contratación pública verde estableciéndose las obligaciones a seguir por los órganos de contratación de las administraciones públicas

asimismo se establece una fiscalidad ambiental donde desde el proyecto de ley se establece la posibilidad de que los ingresos recaudados por las administraciones públicas de la comunidad autónoma integren una partida presupuestaria en sus respectivos

y por último establece además un régimen disciplinario aumentando las infracciones tipificadas como muy graves donde se establece el destino de las sanciones

que es la creación del registro de personas infractoras de normas ambientales en la comunidad autónoma

es necesario articular un mecanismo jurídico que permita que la decisión sobre la implantación de una infraestructura de interés público superior sea proyectada

es decir desde el gobierno vasco es necesario disponer de un mecanismo que permita que en situación de un interés público superior vinculado a los objetivos previstos

repito vinculados a los objetivos previstos en la ley de administración ambiental el gobierno vasco disponga de un mecanismo que pueda superponerse al planeamiento municipal se pretende mejorar la definición de los proyectos sometidos al régimen jurídico de licencia de actividad clasificada y de comunicación previa de actividad clasificada

y mejorar la definición de los proyectos sometidos a evaluación ambiental y eliminación de supuestos con escasa incidencia en el medio ambiente en el caso de la evaluación ambiental estratégica en definitiva es un nuevo marco legal el de la ley inteligente moderno y alineado con los objetivos para proteger nuestro medio ambiente

que presiden la actuación de las administraciones públicas y que sin duda responde a los anhelos de la ciudadanía que demanda soluciones a los problemas actuales en esta materia

buenos días señorías seamos francos con este proyecto de ley de administración ambiental de lo que se trata es de ser europeístas y verdes cueste lo que cueste y caiga quien caiga es la única explicación posible a un proyecto de ley que no ha gustado a nadie no ha convencido ni a la oposición ni tan siquiera a los proponentes pues hay que recordar que en su día el propio pnv introdujo ciento seis enmiendas a su propia ley dándole con ello totalmente la vuelta pero he aquí el nuevo texto que tampoco compartimos

al que se refieren recogiendo dogmas y principios de los programas verdes y ecologistas que hoy por hoy también marcan tendencia en el país vasco

basada en la famosa y manida transición a una economía más sostenible e hipocarbónica como apuntan en la exposición de motivos sí tratan de imponer porque de lo primero que se ocupa el proyecto de ley es de regular los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas unos deberes entre los que nos encontramos el desarrollo de un sistema fiscal ecológico nuevos impuestos para los vascos

tampoco nos sorprende era de esperar más de lo mismo en el año dos mil diecinueve los impuestos ambientales supusieron el ocho coma dos por ciento del total de impuestos en la comunidad autónoma

en impuestos sobre la contaminación impuestos sobre el transporte e impuestos

a partir de esta ley pagaremos mucho más queda claro tal y como decía al principio de mi intervención que su intención es que los vascos seamos más verdes y más europeístas

para vox este no es el camino para la conservación y mejora del medio natural los pasos hacia la preservación del medio ambiente deben darse respetando la calidad y el modo de vida de las personas

en forma de impuestos verdes su obsesiva transición hacia una sociedad hipocarbónica imponiendo la el cambio de modelo productivo

van a obligar a los vascos a destinar ingentes cantidades de dinero para no incurrir en las sanciones que tipifican en este proyecto de ley ese es su propósito criminalizar a los vascos aunque he de decir que tampoco lo ocultan pues en el mismo texto se puede

y paga además el ciudadano vasco en este caso perdiendo sus bienes o derechos que les serán expropiados cuando la utilidad pública o el interés social así lo determinen en qué interés público están pensando en alguna plataforma o empresa multinacional

y estén seguros de que los vascos somos solidarios pero puede decir lo mismo el gobierno quién sale ganando y quién sale perdiendo la balanza una vez más siempre se inclina hacia el mismo lado al lado del gobierno y además de forma sibilina en contra incluso de los ayuntamientos

esta ley por eso señora tapia votaremos no a esta ley eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

buenos días gracias el día de hoy mi intervención pues tendría que ser otra y no voy a hablar de

de hechos los grupos parlamentarios nacionalistas vascos y socialistas vascos que sustentan a este gobierno y que disponen de mayorías suficientes se han empeñado en meter una enmienda

dentro del proceso legislativo de la ley de administración ambiental y les voy a explicar por si no queda claro en qué consiste la triquiñuela a la que se han empeñado y que tiñe de oscuridad una vez más el protocolo

de legislar sobre el proyecto de ley de administración ambiental el procedimiento el procedimiento legislativo es lo que garantiza la plena participación de los agentes legislativos la falta de un debate informado vulnera los derechos de los parlamentarios en su participación

legislativo porque el camino que se recorre para un fin es importante no vale todo

para todos y les voy a demostrar que ustedes han hecho trampas esta vez mire les voy a leer la definición de fraude de ley un fraude de ley es una maniobra o triquiñuela que consiste en la vulneración de una norma jurídica

legal se trata de conductas aparentemente lícitas que producen un resultado contrario a la ley en la que se ampara o prohibido por otra norma y me voy a explicar para cambiar una ley

y justificado con sus correspondientes informes de la cojua y de la comisión de gobiernos locales de euskadi posibilitando que los afectados se pronuncien

y ahora lo que ustedes han hecho el gobierno presenta un proyecto de ley de administración ambiental dirigido a legislar todo lo que tiene que ver con los trámites administrativos sobre el medio ambiente

hablando sobre cómo cuáles son los procesos

si no se cumple la ley pero sin embargo el pnv se ha empeñado en ensuciar

era un proyecto de ley en su base en su fundamento que había que mejorar creíamos que había que mejorar y por eso presentamos enmiendas sin embargo en la enmienda sesenta y uno

se modifica el artículo tres de la ley de ordenación territorial pero se modifica ampliamente esa ley no es un mero cambio

de esta ley que hacen pequeños cambios pero que no modifica sustancialmente una ley son ustedes conocedores del proceso necesario para iniciar una modificación de ley motivación correctamente substanciada los informes a los que me he referido antes

pero no ustedes han introducido una modificación

se han amparado en el artículo ciento treinta y cinco punto cuatro del reglamento del parlamento y se lo voy a leer que dice así las enmiendas al articulado podrán ser de suspensión

se han amparado ustedes y han vulnerado el artículo noventa y noventa y uno de la ley de instituciones locales de euskadi no les voy a leer lo que dicen esos artículos pero

en la que se da un paso más allá para referirse a las enmiendas al articulado de un proyecto de ley y dice

con el texto enmendado resulta también exigible a las enmiendas parciales o al articulado las cuales han de ser además congruentes con aquel es más la famosa enmienda sesenta y uno no esgrimía ninguna motivación o razonamiento que permitiera al menos vislumbrar su conexión con la finalidad del proyecto de ley de administración ambiental

nueva incongruente en lugar de hacerse mediante un proyecto o proposición de ley la falta de información de los parlamentarios que han de trabajar en dicho proyecto saben ustedes por qué cuando se presenta un proyecto de ley este tiene que ser informado por la cojua y por la comisión de gobiernos locales para que quienes tenemos que trabajar en ese proyecto estemos informados y conozcamos los alcances legales a los que nos enfrentamos y sin embargo al admitir la mesa del parlamento la enmienda sesenta y uno del pnv del partido socialista

enmendar y debatir las iniciativas legislativas sometidas a consideración y que pudiéramos hacerlo con cierto conocimiento de causa en suma que tuviera lugar

para saltarse el artículo noventa y noventa y uno de la ley de instituciones locales de euskadi y ahí está la triquiñuela personalmente opino

el partido socialista se queda calladito para seguir en su sitio

para decidir sobre cualquier municipio de euskadi y mire señor alonso le voy a contestar hoy a las preguntas que me hizo el jueves pasado

superior pero aquí en el país vasco aun no están legislados ni regulados

seguramente me hubiesen tenido aquí delante para apoyarles y hacer un buen texto legislativo lo que no apoyo es meter por la puerta de atrás los proyectos de interés superior sin abrir un debate sobre los mismos porque saben ustedes que sobre ellos hay que debatir porque en otras comunidades en las que sí se han aprobado están recurridos al tribunal constitucional verdad lo saben es por todo

que solicitamos se excluya del dictamen de la ley de administración ambiental la disposición quinta con respecto a las enmiendas que hemos conseguido transar son enmiendas que acotan más si cabe las autorizaciones ambientales en zonas protegidas incluyen una batería de requisitos para la obtención de las mismas

de la ley de administración ambiental que es una ley necesaria pero que al final se ha quedado manchada por una manera de actuar no pues un poco

y es una pena que este debate se quede con este resumen que en realidad no beneficia para nada al sostenimiento del medioambiente y a la lucha contra el cambio

hogeita hamalau zuzenketa presentamos treinta y cuatro enmiendas a esta ley

en el texto original de estas treinta y cuatro enmiendas se aprobaron en la fase inicial se admitieron cuatro la más sustancial podría decirse la más trascendental es la que se refiere

anónimos en línea por cierto con lo que se exige ya en la correspondiente directiva europea pero aparte de esto nada más y creemos que esta ley

sigue siendo sigue representando un paraíso

una vez más creemos que con esta ley se pretende que a las empresas

que cumplir con las autorizaciones sea sencillo porque las exigencias y las inspecciones son casi nulas

además denunciar e investigar a las empresas que contaminan se está volviendo cada vez más complicado y

de motivos en euskadi quien contamina no paga y además es que no se le investiga porque tampoco hay medios

con las empresas primero porque las exigencias de las condiciones de las autorizaciones ambientales son mínimas y en algunos casos además son inexistentes permiten que una empresa que emite benceno por la chimenea

una vez al año otras que emiten etileno que es otro agente

ni siquiera tenga un valor límite de emisión y al no tener este límite de emisión pues pueden emitir lo que quieran porque no estarían incumpliendo la ley en las enmiendas que presentamos les pedimos

y que incluso los valores límite de emisión o vertido de estas empresas fueran más estrictos

se cumpliesen los valores límite de contaminación que recomienda la organización mundial de la salud

mucho más bajas muchos menos exigentes sino

y son las que afectan a nuestra salud no se admitió

que no fue posible fue la de exigir a las empresas con autorización ambiental

llevar a cabo una monitorización a tiempo real y en remoto de sus emisiones y vertidos con sistemas de alarma en caso de sobrepasar los límites

después una vez aprobada esta ley tendríamos que considerar avanzar en la posibilidad de llegar a acuerdos

porque creemos que no es posible que en la era de la industria cuatro punto cero

de la digitalización no se digitalicen y se automaticen la monitorización a tiempo real

incineradoras sabemos saben que si

todos los episodios de contaminación que se están llevando a cabo en euskadi que sufre euskadi

del medio ambiente un ejemplo triste de la falta de control de los fallos de control que tenemos fue lo que pasó en zaldibar y si no queremos que se repitan catástrofes

pues el gobierno también como responsable de la vigilancia de estas empresas

para mejorar la manera de monitorizar estas empresas y esta ley sin embargo no hace nada al respecto también bueno para terminar

a esta ley con autorizaciones con condiciones poco exigentes y que no monitoriza a tiempo real la contaminación nos encontramos con una administración que tiene una grave falta de recursos para investigar y para perseguir los delitos ambientales no lo décimos solamente nosotras sabemos que la fiscalía también dio un toque de atención

sobre las escasas personas que componen la ertzaintza medioambiental

ocasiones tienen que archivar denuncias porque no dan abasto

asociaciones ecologistas tienen que acudir al seprona podría decirse en este sentido que en euskadi en la investigación de los delitos ambientales

que no interesa desde luego con esta ley no parece que sea algo que interese y respecto a las denuncias también se reducen

ya que las asociaciones con menos de dos años de vigencia no van a poder denunciar en los juzgados es una medida ad hoc para librarse de denuncias por parte de plataformas que además es que se crean no tienen dos años porque se crean para casos concretos cuando suceden casos concretos como son los de zaldibar zaldibar argituz o gurasos

se crean en momentos puntuales debido a accidentes que se producen graves

prioriza la industria pero desde luego se olvida de la salud de las personas y también

en primer lugar quisiera comenzar con una advertencia a los grupos de la oposición que no cuenten con el grupo socialista para despistar el foco de atención de lo que hoy se trae a consideración a esta cámara

sigan dándole vueltas a tal enmienda o a cuál procedimiento nosotros nos vamos a centrar como siempre en lo que realmente importa

como una pieza más dentro de la necesaria actualización del engranaje normativo para hacer frente a los nuevos retos no pienso dedicarle más tiempo a un debate que ya ha agotado todas sus etapas

y en tantos foros sobre una sola enmienda a un proyecto de ley

a quienes tanto han tenido que ver con el trayecto seguido por esta ley desde sus inicios en la pasada legislatura en primer lugar recordar

así como el paciente trabajo de audiencia negociación y redacción de la infinidad de borradores

en aquel entonces viceconsejera de medio ambiente y el señor iván pedreira director de administración ambiental

como reconocimiento al trabajo realizado por aquel primer equipo socialista y así queden recogidas en el diario de sesiones de este parlamento

determina el derecho de las ciudadanas y ciudadanos vascos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas toda vez

eficiente de los recursos naturales alcanzar estos objetivos requiere de acciones decididas que cuenten con una base normativa firme que les confiera seguridad jurídica

estamos ante una ley que persigue impulsar la corresponsabilidad público privada en la protección del medio ambiente ya que la búsqueda de soluciones en los retos medioambientales requiere de forma ineludible

el sector económico y la ciudadanía en general en definitiva una oportunidad para lograr la mejora de la calidad de vida y bienestar general pretendiendo un decidido cambio de modelo de producción y consumo que impulse una economía circular en la cual el valor de los productos los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos

de la década de los ochenta del pasado siglo la civilización industrial superó por primera vez en la historia

es decir nuestra economía comenzó a consumir recursos por encima de la posibilidad de renovación de los mismos desde entonces hemos estado literalmente comiéndonos el futuro

pero la media como todas las medias de esta huella ecológica

para que todo el mundo viva como un estadounidense medio nos harían falta cinco planetas y para hacerlo como un español medio tres planetas

basado en el hiperconsumo y en el dogma de unos supuestos recursos infinitos es absolutamente insostenible y esta ley a su escala es un paso más hacia el cambio

una ley que abre nuevos caminos para optimizar el uso de recursos alargar al máximo la vida útil de los mismos y minimizar y gestionar su ciclo como residuo

y analizar su reducción la ecoinnovación en productos y procesos que permitan aprovechar las oportunidades de mercado

a la promoción y mejora del medio ambiente todas ellas herramientas enfocadas a los nuevos retos que la sociedad vasca deberá asumir en un futuro cercano

para el cumplimiento de sus objetivos encomendando a las administraciones públicas su promoción y puesta en valor la investigación la educación

entre la ciudadanía y el conjunto de las instituciones actuaciones valores y comportamientos que redunden en la mejora del medio ambiente en esta misma dirección

para la realización de actividades de interés general con contenido ambiental y las acciones de reconocimiento para aquellos que contribuyan a la protección conservación

de la comunidad autónoma es preciso también subrayar

ante la cascada de directivas reglamentos y otros actos de alto contenido técnico emitidos en los últimos años por las instituciones de la unión europea y el gobierno de españa

pero que tenía el riesgo de multiplicar los procedimientos complejos de autorización así como de erigirse en un verdadero obstáculo es por ello

que promueve una aprobación de normas que refuercen el papel de la ciudadanía

y tiendan una simplificación administrativa unificando procedimientos y suprimiendo trámites innecesarios se pretende configurar un sistema

a la vez sea capaz de garantizar la transparencia la eficiencia la economía y la eficacia de la actuación de los poderes públicos hoy traemos a votación

hace apenas un mes esta cámara aprobó la ley de conservación del patrimonio natural hoy se aprobará la ley de administración ambiental

se comenzarán las labores para la tramitación de la ley vasca de cambio climático

que deberá ser de sustentar el entramado legislativo que nos permita definir con la mayor claridad posible las nuevas reglas de juego en las que se tendrán que basar las actuaciones y respuestas colectivas ante el reto que se nos presenta ley tras ley

reflejos de unas instituciones que están a lo que tienen que estar que se preocupan por lo que se tiene que preocupar y que se ocupan de lo que se tienen que ocupar nada más muchas gracias eskerrik asko

algunas de las enmiendas que hicimos a la ley para que se entienda lo que quiero decir a través de las enmiendas

nosotros habíamos propuesto que enmienda dieciocho cuando se vaya a instalar en un municipio una actividad con potencial nocivo se dote a los ayuntamientos de la capacidad de incidir

también en cuestiones de su competencia diferentes a las urbanísticas como ruidos olores vibraciones vertidos calor etcétera buscábamos

incorporar a la ley la capacidad para los ayuntamientos de pedir la revisión de oficio de las autorizaciones ambientales para las actividades que operan en su municipio

de actividades sometidas a autorización ambiental buscábamos

la creación de un servicio de apoyo especialmente en los municipios de menor capacidad para técnicamente las labores de vigilancia inspección de las actividades clasificadas y otras tantas

así como nuestra enmienda medida más importante en defensa de la participación popular y ciudadana la regulación en esta ley de las consultas ciudadanas

ahí hay un modelo es un modelo de participación y de apoyo a los municipios con menos recursos de colaboración interinstitucional de auzolan si quieren propuestas que se han topado con un muro

con una tapia hay otro modelo el suyo se refleja bien en esta ley y va en un sentido completamente opuesto y se culmina

la obligación a los municipios a través de los proyectos de interés público superior a doblegarse a los planes impuestos por lakua dos maneras de hacer las cosas evidente

pero que se ha visto también en el proceso porque el partido nacionalista vasco en los debates que se han dado en los pueblos

y en detrimento de los municipios a decir a sus cargos que está bien que su planeamiento municipal se suspenda y adapte a lo que diga lakua a hacerles decir que sí que está muy bien que lakua se desde lakua se limite la capacidad de ordenar el municipio es decir

se le está haciendo decir por ejemplo a gorka urtaran alcalde de gasteiz y presidente de eudel y por lo tanto de los intereses de las competencias municipales

y a partir de hoy arantxa tapia pueda declarar por ejemplo

porque se podría con esta ley y a partir de ahí el urbanismo de gasteiz adaptarse a esto y que la denegación de permiso que el firmó por ser el pozo incompatible con el plan general no valdría ni para hacer puñetas eso le estáis haciendo decir a vuestros alcaldes y a los diputados por cierto

nace con el déficit democrático de no haber dado la palabra a los municipios de no haber dado ni a este parlamento ni a nadie la opción de analizar sus consecuencias y nace

ambiental hoy nace la ley tapia una ley que cercena competencias municipales como el urbanismo una ley que renuncia a la ordenación del territorio una ley lesiva lesiva que se suma a otras leyes nefastas de nombre propio como lo fue en su día la ley corcuera o la ley wert y que como la

entra en lista prioritaria de leyes a derogar y termino si lo que pretendíais con esta modificación de la ley de ordenación del territorio era generar una llave maestra

a determinados proyectos hoy vais a conseguir todo lo contrario cada proyecto de interés público superior aprobado será

ya fueran débiles o consistentes se le va a sumar el de la imposición y este argumento va a ser inapelable porque eso es lo que conlleva la aprobación de esta ley

a la imposición miopía política eso es la ley tapia eskerrik asko otero jauna

de las planteadas por podemos efectivamente que también mejoran la ley y ha sido una pena no haber podido alcanzar acuerdos de transacción en otras seis

podemos ha dicho la portavoz de podemos ha dicho que esta ley era mala

que es un paraíso para las empresas contaminantes podemos marcó desde el minuto uno cuáles eran sus dos líneas rojas sus dos temas e intentamos llegar

pero una la medición en continuo de actividades en la autorización ambiental integrada

y que por lo tanto no se podía aplicar la medida que proponía

y además ocurre que los problemas que se plantean en las emisiones normalmente se plantean en las emisiones difusas lo cual hace técnicamente inviable la pretensión de podemos ahal dugu

intentamos aclararle una y otra vez que las recomendaciones de la oms no establecen límites de emisión sino límites de inmisión

y que por lo tanto difícilmente tenía encaje en el texto legislativo el traducir porque sí las recomendaciones de la oms en límites de emisión

ocurría que creo que también lo comentamos que ni siquiera tiene establecidos limitaciones de emisión eh bildu propuso treinta y ocho enmiendas votamos sí a tres

ellas hubieran mejorado la ley pero con la ya famosa enmienda sesenta y uno topamos y no hubo manera

y sí llegamos a más acuerdos con el partido popular de las más o menos noventa y tres enmiendas que presentó aceptamos una treintena y transamos otras diez y todas ellas consideramos que mejoran el texto de la ley

una buena ley y ahora es una mejor ley hobeagoa

pues mire hoy es un día afortunado para quienes quieren imponer su forma de actuar a los municipios y a las diputaciones forales

a los proyectos estos o del gobierno o del pnv pero qué es lo que hay detrás de estos proyectos para que los alcaldes

de este disparate porque si ustedes hubieran dejado que los municipios y las diputaciones comentaran

que la ley de administración ambiental es una ley que se ha mejorado claro que se ha mejorado lo único que la ha fastidiado es admitir la enmienda sesenta y uno de las maneras que se ha admitido porque claro que hay que debatir

no son mentiras son hechos existe una realidad en el procedimiento que se ha llevado a cabo para desarrollar

y no son mentiras me gustaría saber cuál es el motivo por el cual los alcaldes del partido nacionalista y del partido socialista que aquí en esta cámara han presentado esa enmienda se posicionan en contra de la misma pues porque se posicionan en contra

a no poner en duda lo que están haciendo sabiendo que él mismo

firmó una orden para decir que no se ajustaba al ordenamiento urbanístico de vitoria entonces qué es lo que está sucediendo hay algo que se nos escapa por qué tenían ustedes esa necesidad de meter tan rápido los proyectos de interés superior el tiempo

si existía un problema si existe un problema de residuos que además somos conocedores que existe un problema con los residuos en el país vasco tendríamos que haberlo traído aquí teníamos que haber debatido

más limpia simplemente eso los señores del partido socialista solo hablan de lo que ha sucedido con la ley de administración ambiental que es salvando

una ley que ha sido mejorada y es una buena ley para el medio ambiente en euskadi pero el problema está en cómo han impuesto ustedes los proyectos de interés superior

la legislación de estos proyectos ese concepto no estaba incluido en ninguna ley y menos en la ley de ordenación territorial

imponen los proyectos ahí será donde nos encuentren enfrente necesitamos que los municipios se pronuncien y que tengan un poco de opinión por lo menos con lo que respecta

pero sin el pueblo da lege honen lelo perfektua

creemos que en realidad esta ley lo que sirve el objetivo o los objetivos de esta ley son primero

a los municipios segundo que en algunos de estos pips se beneficien ciertas empresas que son las de siempre y

tercero otro objetivo que estas empresas tengan estas y otras tengan las mínimas exigencias ambientales monitorizaciones a tiempo real o vigilancias posibles para qué

y cuarto objetivo claro de esta ley que es que ante la existencia de denuncias por infracciones o delitos ambientales prohibir

por una parte y por otra parte no dotar a la ertzaintza de recursos suficientes para que puedan investigar

son cuatro objetivos importantes de esta ley que no podemos compartir y como decía anteriormente por eso precisamente votaremos en contra eskerrik asko

no entiendo no entiendo dónde puede estar el problema

y yo le respondería como becker

el poeta en los ojos sí y le dejo un pie de nota a la señora arrizabalaga que luego

faltas de respeto que se imagina para justificar sus diatribas en este punto el otero va a hacer un pequeño tuteo que no es falta de respeto sino que es amor a la paráfrasis poética insisto bécquer señora tapia

decía becker cuál es el problema me pregunta usted cuál es el problema me dices mientras clavas tu pupila mi pupila en tu pupila vida azul cuál es el problema y tú me lo preguntas

el problema eres tú el problema es su manera de entender el interés social medioambiental el problema

el problema es que a ustedes les sobran las competencias municipales

portal portalez portal portal guztietan egin zen

la mesa vulneró los derechos de los parlamentarios o sea por aclarar y cuando un grupo parlamentario presenta una proposición de ley

qué dice la cojua en ese caso qué la lile en ese caso señora larrea

pero en todo caso no quiero desvelar entretelas y no quiero decir cosas que siendo verdad no van a ningún sitio pero

su intervención eta

la del pnv dijo no haberlas mirado con mucha atención ez

poner lo que nos diera la gana bi horiek gezurrak

podrá declarar armentia como pip o pips hobeto esanda cuando todo el mundo sabemos que

que no hay nada de exploración ni explotación de gas y cuando todos sabemos que hace bastante tiempo ya que se ha aprobado una ley

que prohíbe explícitamente este tipo de proyectos sin embargo se utilizan habitualmente para alimentar determinadas argumentaciones

sí de la manipulación eta oso zikina iruditu zait baita

por parte de las instituciones se dice y se anuncia a bombo y platillo la necesidad de la investigación y el desarrollo pero pocas veces se cuenta

es decir precariedad inestabilidad y un duro camino a recorrer por las investigadoras por ello si se habla de investigación se tiene que hablar de los investigadores

así como también sueldos dignos que los investigadores predoctorales no lleguen a ser mileuristas durante los primeros dos años de investigación dista muchísimo del país puntero que el gobierno vasco nos quiere vender egoera aldatzeko eta ikerlarien lan baldintza duinak bermatzeko asmotan

programa beka zein estrategiak garatuko badira lo que hoy saldrá adelante no es ni mucho menos una victoria y eso lo tenemos muy claro

tampoco es un compromiso claro pero sí que plantea una nueva dirección y es que conseguimos que las vidas de las investigadoras estén en el centro de la investigación y sobre todo

para seguir el camino hacia sueldos dignos los sueldos que las investigadoras se merecen y algunos todavía no quieren subir

señorías bien una cosa es cierta los sueldos de la mayoría del personal investigador son manifiestamente mejorables en este país

desarrollo futuro e invertir en investigación es invertir en el futuro de euskadi sin embargo

no reconocemos suficientemente su extraordinario papel ni los años de estudios necesarios para poder dedicarse a la investigación

que se incrementen los salarios del personal investigador de hecho nosotros hemos presentado

de la comunidad autónoma el proyecto de presupuestos incluimos múltiples enmiendas parciales

y es que efectivamente los salarios ofrecidos a los investigadores en euskadi son bajos en relación a otros sectores de actividad y suponen un agravio comparativo que se perpetúa a lo largo de su vida laboral dicho esto también hay que decir que

también diferenciar la situación de los investigadores predoctorales de los ya doctores

del valor del título de doctor el esfuerzo el tiempo que conlleva son

hay que analizar en cuanto a la situación de los investigadores post doctorales hay que decir que es peor que la de los predoctorales las ayudas a personal postdoctoral llevan congeladas desde el dos mil dieciocho congelar el sueldo de los investigadores postdoctorales no es la forma de progresar en la adecuación de los salarios eso está claro pensamos que los investigadores pre y post doctorales no están cobrando lo que se merecen

un incremento sustancial de las retribuciones

pero hay una razón evidente los investigadores son nuestro futuro son lo mejor de nuestra juventud en muchos casos y deben estar adecuadamente reconocidos

nosotros como decía antes tenemos un importante número de enmiendas

que bien podrían dar un acelerón desde luego a lo que va a tratar de ser el punto de partida o el pequeño paso

con los grupos que apoyan al gobierno nosotros tenemos una serie de enmiendas que pueden dar ese paso definitivo en relación con el apoyo y los incrementos de retribuciones nosotros hemos hecho una enmienda a la totalidad la primera en el marco

dotación presupuestaria para los programas predoctorales postdoctorales y programa de movilidad del personal investigador para incrementar el salario del personal investigador hemos presentado

y el segundo habla de las tasas de los doctorandos

algunas tasas que son absolutamente absurdas por eso nosotros hemos propuesto y hemos visto que se ha recogido en la enmienda de transacción

a todo el proceso de obtención del título de doctorado matrícula de cursos de doctorado apertura del expediente matrícula de tutoría gastos fijos de tutoría traslado de expediente académico defensa de tesis doctoral expedición de título de doctor etcétera

y trabajo en la universidad del país vasco nosotros pensamos que esto

es la base de la enmienda de totalidad que nosotros presentábamos

la enmienda de transacción que han firmado recoge la literalidad de la segunda parte de nuestra enmienda y sí que es cierto que vemos reflejado de alguna manera subir las remuneraciones de una manera

claro hay una especie de impulso de pequeño paso como se decía antes está claro que también

y lo seguirá haciendo nosotros lo que tenemos que hacer ahora es desde luego analizaremos lo que se aprueba y votaremos a favor

a ver y a seguir de cerca los pasos de la universidad y del departamento para que den en este sentido y para que desde luego se logre lo que

del personal investigador como ya hemos explicado muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

tasa altuak daudela eta baita ere adibidez en el caso de las personas que tienen carga docente también tienen una carga

gaixotasun mental askoren atzean dagoen asuntu bat da más del treinta y cinco por ciento de los doctorandos

a profesionales de la salud mental el ochenta por ciento también

dice que tiene o está en situación de agotamiento emocional por tanto

a la salud la posición ante esta propuesta proposición no de ante esta pnl de mi grupo es bastante complicada en el sentido de que

de origen introdujimos algunas enmiendas de adición pero no se han tenido en cuenta en esta transacción no nos vamos a oponer al acuerdo al que se ha llegado pero sí que nos parecen insuficientes

salarios pero también hay que analizar estamos de acuerdo hay que calcular también

hay que asumir compromisos concretos y esta ya se ha dicho por la parte proponente que es insuficiente porque no se blinda el incremento salarial no hay compromisos concretos de subidas y análisis y sí de que se va a subir no sabemos en cuánto se han citado también

se pactó en los presupuestos de dos mil diecinueve con mis compañeros de podemos y no se cumplió ese acuerdo por parte

del gobierno por tanto más allá de compromisos

sin compromisos claros de plazos y de incrementos pues creemos que es totalmente

que el gobierno vaya a analizar y vaya a proponer mejoras pero hay que saber en qué sentido va a ir

de la upv y vuelvo a decir eso también ha quedado fuera había una mención muy clara a un programa

para eso la universidad del país vasco necesita más

vuelvo a decirlo necesitamos que el gobierno vasco asuma las cantidades adeudadas al colectivo investigador desde la entrada en vigor del epif ya se ha mencionado

se homogeneizaron las retribuciones salariales y se incrementaron de forma

no suficiente pero en muchos casos no se aplicarán las subidas de forma inmediata desde la entrada en vigor estatuto y gran parte del colectivo investigador de la upv se ha quedado sin cobrar parte de lo que le correspondía esto ha traído lógicamente más que malestar cabreo entre la gente a la que se le debe parte

de doctorandos de la universidad del país vasco a través del sindicato lab ha judicializado la cuestión y aquí tenemos el tribunal supremo del país vasco valida la interpretación de lab la upv debe pagar lo debido al personal investigador predoctoral esto salió el veintiséis de noviembre si no me equivoco y vuelvo a decir la universidad del país vasco que no estamos de acuerdo con el recurso que puso

para pagar lo que se les debe a estas personas a estas investigadoras horrexegatik berriro diot ez dugu sinatu eh bildu

de un recorte en el año dos mil trece que no se ha revertido por parte del gobierno vasco que llegó el epif y que en todas las convocatorias no se ha revertido que se incumplió

el salario de los y las investigadoras y por tanto y luego también porque nos da bastante

la última frase del primer punto que es en la línea con la disponibilidad de recursos porque la disponibilidad de recursos

lo va a determinar un señor que no está presente aquí que es el señor azpiazu que tiene otras prioridades que no son las de subir los salarios a los investigadores predoctorales como hemos visto en el proyecto de presupuestos

según quién porque recursos hay suficientes para cubrir las necesidades de este personal si sobre todo estamos de acuerdo con las palabras de los anteriores

de investigación más allá de reconocerlo hay que pagarles lo que sería de justicia

vuelvo a decir no hay ninguna referencia a las investigadoras beneficiarias de convocatorias de la universidad del país vasco predoc y postdoc

por una parte la aportación a la universidad del país vasco por otra parte la ayuda a la formación de investigadores en áreas generales y la de otros dos millónes de euros a las ayudas de perfeccionamiento de doctores por tanto creo que estamos en un momento importante animo a que si pudieran suscribir estas enmiendas si de verdad

entre el gobierno y eh bildu que haya una referencia directa a que este año en el presupuesto de dos mil veintidós haya una subida podríamos discutir sobre la cantidad para

en el acuerdo de presupuestos del año dos mil diecinueve

las ocasiones que en este parlamento hemos tratado bien en pleno o en comisión este asunto no se lo digo como reproche se lo digo simplemente para

una especial trascendencia pero como le digo no ha sido una ni dos ni tres las veces que hemos hablado de ese tema pero creo que también es de justicia como ya lo dijo el consejero en la interpelación del pleno de control es bueno hacer una visión de conjunto sobre cómo está la situación

dato revelador del compromiso y la implicación del gobierno con la ciencia y no es el único esta es la comunidad autónoma que más invierte en actividades de investigación y desarrollo el dos por ciento de nuestro producto interior bruto

millónes en el presupuesto del diecinueve según datos del eustat este esfuerzo tiene además resultados por la calidad y la importancia de la investigación que se realizan

el sesenta por ciento de la producción científica en euskadi se ha realizado en revistas científicas de primer nivel

por tanto el personal investigador de lo que estamos hablando hoy se configura como la pieza clave en estos resultados y por ello se van a seguir formando una cantera de investigadores

en las tres universidades vascas un diecisiete por ciento más que el año previo en cuanto al aspecto concreto de las condiciones específicas del personal investigador me gustaría poner de manifiesto las mejoras que ya se han realizado en las últimas convocatorias para reforzar programas predoctorales postdoctorales y del personal investigador doctor

por ciento el presupuesto destinado a la financiación de los programas de formación de investigadores que se incrementarán un cinco por ciento el número de beneficiarios

y en el ámbito de la investigación predoctoral la convocatoria dos mil diecinueve dos mil veinte recogió ya un presupuesto con un promedio cercano al diez por ciento en el salario del personal investigador con una duración de cuatro años

hasta los seis años en el caso de personas con discapacidad

y en el ámbito de la investigación postdoctoral la convocatoria veintiuno veintidós se aporta una ayuda complementaria al personal de diez mil euros durante los dos primeros años para desplazamiento y estancia en el extranjero

para el personal investigador en fin lo digo

un problema de una visión exclusivamente negra tiene como todo luces

y como es evidente que en los momentos actuales no se puede negar la importancia que tiene la investigación

como los que el mundo está viviendo con crisis pandémicas crisis climáticas

y en todos esos casos a qué se recurre a la ciencia y a la investigación y aunque puedan parecer temas que trascienden

es una forma de dibujar la tremenda importancia que la ciencia y la investigación tienen en este mundo y lo van a seguir teniendo cada vez más para aportar certezas no especulaciones

con toda seguridad no estaremos haciendo lo suficiente no lo niego tendríamos que hacer bastante más en este tema a todos los niveles porque en este mundo que se nos avecina tenemos que tomar muchas decisiones que tendrán que estar basadas en informes científicos

no en especulaciones que no es lo suficiente el esfuerzo realizado con toda seguridad nunca será suficiente el esfuerzo que se hace en investigación pero eso no quiere decir

los esfuerzos que se están haciendo para ir actualizando progresivamente la cuantía de las ayudas en este capítulo y la adecuación en la remuneración del personal investigador se ha producido ya un incremento en las retribuciones para la última convocatoria

que es otro elemento importante a usted le parecerá que no es suficiente probablemente a mí me parezca lo mismo que a usted pero creo que también es de justicia recalcar que se ha ido mejorando

gustado que hubiera sido con más potencia probablemente teniendo en cuenta que este es uno de los elementos clave para cualquier sociedad moderna la investigación es absolutamente fundamental

más queda en evidencia que la ciencia y la investigación son dos anclas que nos fijan en la realidad y que nos aportan soluciones y salidas a este mundo en el que vivimos la propuesta que hemos firmado con el grupo nacionalista quería resaltar la importancia de la investigación y poner en evidencia que hay un compromiso del gobierno para ir incrementando

y por lo tanto tendríamos que hacer una reflexión global trascendiendo exclusivamente de la comunidad autónoma en la que estamos para hacer también una apuesta global porque esto sí que afecta al planeta en el que vivimos para salir de las situaciones de zozobra que tenemos encima de la mesa

y para eso la ciencia y la investigación son absolutamente fundamentales

en un determinado grado y es muy lícito hacerlo nosotros también podemos decir que estamos insatisfechos

pero creo que es un esfuerzo que merece la pena ser reconocido y yo quiero felicitarme por el acuerdo que hemos alcanzado con ustedes

popular pero también le digo una cosa ustedes acaban de llegar a un acuerdo presupuestario ahora con el gobierno para los presupuestos del dos mil veintidós

esta parte del salario del personal investigador que no ha formado parte del acuerdo

a esa negociación presupuestaria ese llamamiento se lo hago también al resto de los grupos de la cámara

ese incremento del personal investigador y de que en ese momento podamos felicitarnos todos por esa situación muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

hau da ikerkuntzari bultzada ematea eta ikertzaileei gure babesa erakustea la investigación y por tanto la labor que desarrolla el personal investigador

productiva y avanzada en euskadi los datos los hemos conocido y lo ha comentado también el señor pastor a través del informe sobre la ciencia en dos mil veintiuno que analiza los años de los resultados del año anterior

cuatro de las conclusiones que resalta este análisis entre las cuales está que el trabajo del personal investigador ha alcanzado por primera vez en euskadi las siete mil quinientos veintitrés publicaciones eso es un trece por ciento más que en el año anterior

se han duplicado las producciones científicas realizadas por el personal investigador

es para celebrar también se constata que euskadi es líder en retorno per cápita de fondos europeos en este caso se constata que en el periodo dos mil catorce dos mil veinte se han captado un total de ochocientos cincuenta millónes de euros para la investigación también que cerca de dos de cada cien personas en euskadi se dedican a labores en torno a la investigación y el desarrollo esto es también positivo porque por primera vez llegamos a las veintiuno mil personas ocupadas en labores de investigación y desarrollo y

con mayor inversión en actividades de investigación y desarrollo como porcentaje en este caso de nuestro

otros factores que repercuten directamente en las condiciones laborales del personal investigador encontramos la inversión que se realiza en torno a infraestructuras donde el personal investigador desarrolla su labor científica o el equipamiento con el cual desarrollan esta labor en este sentido la previsión también para dos mil veintidós es de un aumento del dieciséis por ciento del presupuesto alcanzando los ocho coma cinco millónes de euros de inversión en torno a infraestructuras científicas

a este objetivo otras políticas públicas que inciden en este caso sí directamente en el salario del personal investigador son por un lado la convocatoria predoctoral que ya para el curso dos mil veintiuno dos mil veintidós vio incrementado su presupuesto en torno a trescientos mil euros más lo que ha supuesto que

el personal investigador predoctoral haya visto incrementados sus retribuciones

en este caso a través de la orden para el curso dos mil veintiuno dos mil veintidós

novedades como puede ser una la ayuda complementaria para gastos durante los dos primeros años en este caso para reducir el impacto económico que tiene el desplazamiento y la estancia en el extranjero o el incremento del seis por ciento de la ayuda en el tercer año para mejorar así la remuneración que reciben estas personas con experiencia internacional

por último también creo que cabe destacar en torno al ecosistema

otros programas como pueden ser el de movilidad del personal e investigador doctor que en este caso también desde el dos mil diecinueve

su presupuesto sus dotaciones a percibir por los beneficiarios de esta

hablamos del periodo dos mil veintidós dos mil veinticinco y para ese periodo se prevé una inversión de cuarenta y dos millónes de euros es decir un veinte por ciento más de este programa destinado

la inversión que se realiza en torno a las infraestructuras donde se desarrolla la labor de las personas investigadoras los equipamientos que utilizan para desarrollarla

tienen una repercusión y dejan claro que el aumento o la tendencia a ir aumentando estos programas por parte del gobierno vasco y por tanto la apuesta que realiza en torno a la investigación

es clara y firme y en eso desde luego podemos constatar que el gobierno vasco está con la investigación y con el personal investigador constatada por tanto esa apuesta como digo en el acuerdo transaccional de hoy instamos por un lado como se ha dicho al gobierno a continuar

en su conjunto y partiendo además de un análisis de la situación actual para posteriormente ver cuáles pueden ser las medidas a aplicar a partir ya del próximo curso bestetik

al parlamentario pastor se podría haber hecho más esfuerzo o se podría haber metido este tema también en el debate presupuestario

cuando nosotros planteábamos en la primera propuesta

en este gobierno pudiesen contemplar esos contenidos en este acuerdo y este acuerdo fuese muchísimo más relevante o muchísimo más importante y más más general en ese sentido para plantear una vida bastante más digna

mila esker mahaiburu andrea mila esker mahaiburu andrea eguerdi on guztioi este mismo año el cuatro de marzo en este parlamento se aprobó una pnl presentada por mi grupo parlamentario en la cual se hacía referencia a los problemas de la infancia y la adolescencia

en aquella ocasión nos centramos en el ciberacoso por su importancia y su carácter general que conlleva pero

ellos viven realidades mucho más amplias dada

los derechos y el bienestar de la infancia así como las problemáticas a las que se enfrentan debe ocupar un sitio central en la agenda política los niños

para ellos la presencia en internet es constante e incluso una necesidad vital lo malo es que a las problemáticas naturales de la edad gracias a la tecnología hay que añadir un montón de situaciones nuevas en un espacio no controlado han pasado muchos años desde que comenzó internet y la expansión de las redes sociales y creemos desde nuestro grupo parlamentario que ya va siendo el momento de medir y evaluar

tanto para lo bueno como para lo malo es necesario permitir a la juventud acceder a las experiencias positivas que aquí se dan hacer amigos tener acceso a la información pero no podemos tampoco ignorar los riesgos que

igual que tampoco podemos dejar de evaluar estas situaciones

fuera del acuerdo la evaluación que el grupo proponente

cuando es una de las claves más importantes y que dará paso a las siguientes medidas

las voces de los niños y niñas situación esta que también se ha quedado fuera de la transacción tienen derecho a expresar sus opiniones sus inquietudes a la hora de decidir las políticas que a ellos les afectan queremos insistir en la necesidad de que se hagan

y que se hagan incorporando la voz y las opiniones de la infancia y la adolescencia los niños y niñas adolescentes son actores sociales con capacidad de agenda lo cual implica que son copartícipes de la realidad la cual comparten

y así lo dicen las conclusiones de un informe elaborado por la plataforma de la infancia sobre las actitudes de los niños niñas y adolescentes

la mayor demanda de esta población juvenil es que quieren ser partícipes de este debate en igualdad de condiciones porque la juventud piensa que en el debate existen muchos perjuicios que les sitúan como personas sin criterio

cuando en realidad somos los adultos quienes tenemos una

tampoco se trata de ver quién tiene razón sino de ver que es necesario un consenso intergeneracional porque nosotras también tenemos dificultades a la hora de hacer valer nuestros derechos digitales a nosotras también nos cuesta

nosotros también tenemos mucho que aprender en la transacción del cuatro de marzo

en la necesidad de realizar un protocolo y una recogida de datos pero dado el calibre de la situación creemos que no solo es necesario un diagnóstico puntual

este ámbito a la agenda de las políticas de la infancia por ello en nuestra enmienda proponíamos crear un servicio dentro de ikusmira para que de manera permanente

y también le instábamos a la evaluación y la implementación de mejoras en el marco de bizikasi no creemos que el servicio sea el marco adecuado para realizar lo que se propone en la transacción teniendo como tenemos

por un lado le estamos dando más carga de trabajo al servicio sin incrementar sus recursos y por otro estamos diversificando sus funciones cuando era un servicio muy especializado en escucha y atención a los menores ahora también va a ser el servicio el encargado de elaborar las guías

claves necesarias para atajar los problemas derivados en las nuevas formas de socialización nuevos conceptos de intimidad y privacidad han llegado

y para ello es necesario dotar a las familias de herramientas para poder relacionarse con este nuevo espacio por eso

pero también estamos seguros que es necesario una mirada integral y transversal para que sea desde todos los departamentos del gobierno vasco

y de esta manera estableceremos medidas en materia de usos problemáticos de juego online como lucharemos contra el sedentarismo crearemos espíritu crítico o erradicaremos los comportamientos que constituyen

y este trabajo no es responsabilidad exclusiva de las familias o de los propios niños antes como ahora hacíamos un especial hincapié en la necesidad de implicar al sistema educativo

educativo es la clave para avanzar hacia una sociedad crítica y

en capacitar a los alumnos en el manejo de las herramientas necesarias

no le hemos dado la misma importancia en dotarles de la capacidad crítica necesaria para entender el entorno digital antes se ha dicho de incluir la filosofía que se estaba dejando de lado pues estamos totalmente de acuerdo en el proyecto conectados

solo un veinticinco por ciento han recibido clases de cómo mirar las pantallas con un pensamiento crítico y de estos solo el dos por ciento de los

así lo dice el estudio internacional de alfabetización informática de

y dice que hay que implicar a la sociedad educativa en este pensamiento crítico y también dice este mismo estudio que este dato no es igual para todos los grupos de población la brecha socioeconómica es un factor importante

en este informe se dice que los estudiantes con mayores niveles socioeconómicos y con más dispositivos en casa tienen una información informática significativamente más alta en alfabetización que aquellos que tienen un padre o una madre con una licenciatura sacan hasta treinta y uno puntos más que los que no lo tienen

en la y creemos que no podemos dejar pasar la ocasión de insistir en los servicios del programa

y no creemos que estos programas se tengan que mantener al margen de los trabajos que entendemos se deberían centralizar en ikusmira tanto para la promoción de internet como para la difusión de las guías que aquí estaban

entendemos que hay que asegurar que las familias en situación de vulnerabilidad y afectadas por la brecha digital no se queden excluidas de la oportunidad de ser partícipes de este empoderamiento digital

tiene que ser una iniciativa que tienen que adoptar todos los centros de una forma también

para que desde ella se detecte y se prevenga el ciberbullying

de forma activa y proactiva en nuestras manos está el dotar a los más jóvenes de pensamiento

ante la información que se les va llegando e incluso ante la vida misma y es que trabajar dicho pensamiento crítico en los más jóvenes es una tarea fundamental en el desarrollo personal

era que los jóvenes fueran capaces de tener una opinión propia con respecto a una situación

creo que con esta transacción que se ha llevado a cabo
no se va a cumplir dicho objetivo eskerrik asko angulo jauna euskal sozialistak

sí gracias presidenta hoy debatimos sobre el uso de tecnologías digitales

el uso de las tecnologías supone un aporte muy importante tanto a nivel emocional como social para

les ayuda a hacer o mantener amigos a sentirse acompañados etcétera

los socialistas vascos este es un buen debate porque hoy en día casi todas nuestras acciones y la de nuestros niños niñas y adolescentes tienen un reflejo en el mundo virtual y por ello en el informe

que ha elaborado este año en el dos mil veintiuno sobre el impacto de las tecnologías en la adolescencia

pero también considera necesario añadir una erre

porque considera mejor hablar y decir tecnologías para la relación la información y la comunicación y hay que destacar que la pandemia y la convivencia durante la misma

con una educación vía on line ha producido también exponencial de las competencias digitales de nuestros niños niñas y adolescentes y somos conscientes de que el uso de las tecnologías digitales es fundamental dentro de su aprendizaje y desarrollo integral muchas oportunidades de información de relacionarse de trabajar en clase para jugar

todo un mundo de riesgos que no podemos obviar y que es necesario que conozcan para su propia seguridad y no solo lo deben conocer nuestros niños niñas y adolescentes sino también

y sus centros educativos entre esos riesgos podemos hacer referencia al ciberacoso el chantaje o la sextorsión el sexting o contacto con personas desconocidas sentirse discriminados o excluidos el grooming o nueva forma de pederastia vinculada a

el acceso a contenidos inadecuados a su edad posibles adicciones a videojuegos o al juego

y todo eso a través de los móviles ordenadores o tablets las cifras son claras en el informe

el noventa y ocho coma cinco por ciento de los adolescentes está registrado en alguna red social y de ellos el sesenta y uno coma cinco por ciento tienen más de un perfil en una misma red social uno de cada diez menores juega o apuesta

y puede llegar a convertirse en un ludópata y uno de cada tres estudiantes españoles podrían tener ya un uso problemático

dos de cada diez adolescentes podrían estar siendo víctimas de ciberacoso y cuatro de cada diez adolescentes están conectados para no sentirse solos

este informe de unicef muchas familias podrían estar teniendo cualquiera de estos problemas antes indicados lo que hace que tenga una importancia realizar un análisis de los mismos por parte de las administraciones

un escaso nivel de supervisión por parte de los padres y madres porque no son conscientes de la importancia que tiene el acompañamiento de nuestros hijos

solo un veintinueve coma uno por ciento de los adolescentes señalaba que sus padres o familiares les ponían algún tipo de normas o límites en este uso de internet y las pantallas y eso hace

la labor de prevención de información y formación el gobierno vasco es consciente de su importancia por eso en los últimos años ha ido tomando diferentes medidas en la materia en el dos mil quince elaboró pedagógica para trabajar la educación en las nuevas tecnologías promoviendo un uso responsable preventivo y educativo

en dos mil dieciséis se publicó una guía dirigida a padres y madres con el fin de informarles y formarles en cómo pueden educar a sus hijos hijas adolescentes en su uso

con la escuela vasca de deportes y los directores de deportes y durante la pandemia

no solo un programa para ayudar a los alumnos a realizar todas las tareas en sus hogares confinados sino que además se realizaron también

esos conocimientos digitales y poder acompañar a sus hijos y también por parte de la consejera de igualdad justicia y políticas sociales la señora artolazabal ya se ha anunciado que para el año dos mil veintidós

guías actualizadas para familias sobre

y también consejos para cuidar esas primeras relaciones de los niños

y en el dos mil veintidós también se hará un análisis de las diferentes redes sociales y aplicaciones en función de las edades de esos niños niñas y adolescentes para que conozcan las pautas de seguridad de su uso y poder mostrar las herramientas de uso familiar

de la ley en la próxima ley de derechos de la infancia y la adolescencia se impulsarán iniciativas de sensibilización y concienciación y medidas de

de trastornos de salud mental de adicciones o conductas problemáticas y además

la violencia hacia la infancia y adolescencia que abordará los problemas que conlleva un uso inadecuado de las tecnologías digitales

en su intervención en la interpelación del pasado veintiséis de noviembre de este año

de que la tecnología avanza muy rápidamente y por eso adquiere especial importancia y especial valor la necesidad de en la formación en espacios educativos también en la formación a familiares

a nuestros menores para que nuestros hijos e hijas aprendan a tener su propia autonomía redes mejorando su experiencia de una forma segura es fundamental contar con estas herramientas pero también es importante

contamos para poder movernos con seguridad y por eso se ha venido trabajando en esta línea y se va a seguir trabajando en la misma y además esto cumple las recomendaciones

que venía y que realiza unicef dentro del informe elaborado este año es por ello por lo que yo

por el acuerdo alcanzado también con el grupo proponente en esta iniciativa porque creo que va en la línea que ya he indicado en mi intervención y que además va en la línea

de todo lo que estamos presentando y planteando los distintos grupos que estamos interviniendo hoy en esta cámara en esta

recoge compromisos importantes para seguir avanzando en ello y recoge la necesidad de actualizar

los materiales que tiene a disposición la ciudadanía de una forma muy que no voy a entrar ahora a detallar porque no tengo tiempo y también teniendo en cuenta diferentes perfiles que es importante no solamente

y adolescentes para que puedan hacer ese uso seguro responsable y crítico para que puedan aprovechar todos los beneficios que adquieren desde el uso del mundo

responsabilidad y unos conocimientos que le garanticen una seguridad

y también el perfil de los padres y madres que deben desempeñar ese papel de acompañantes digitales como lo hacemos también

facetas diferentes de la vida de nuestros niños niñas y adolescentes y además incluye la necesidad de una campaña de concienciación sensibilización e información importante yo creo que en el fondo estamos todos los grupos que hemos intervenido como he dicho estamos completamente de acuerdo en muchas de las cuestiones que yo he dicho nos separa con el grupo elkarrekin podemos la forma de llevarlas a cabo

recogido un montón de propuestas un montón de compromisos ellos

y en muchos de los puntos también de su propuesta coinciden plenamente también con lo que está recogido en la enmienda

para que votaran a favor de la misma porque yo creo que es positivo para seguir
avanzando nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

muchas cosas en relación con esta cuestión que nos plantea la señora martinez nosotros compartimos con todos los grupos de esta cámara la preocupación por los efectos del uso inadecuado de la tecnología sobre todo

tiene entre niños y adolescentes y que ya ha sido descrito en las intervenciones somos conscientes de que está generando diferentes problemas también se han mencionado problemas de adicción conductas inadaptadas el bullying

problemas de salud nosotros dicho y mi compañero el señor gil también lo ha dicho en otras ocasiones en esta cámara

no se limita al ámbito de la tecnología pero que lo agrava porque permite el acoso ese que no se limita solo al ámbito físico de la escuela a ese acoso

sociales pero lo cierto es que no solamente el bullying hay problemas muy graves asociados a ese

es necesario analizar cuando menos estamos de acuerdo en que el gobierno debe tomar

tendentes a reducir esas consecuencias no deseadas algunas como la realización de estudios o la publicación de guías bueno ya

derivado desde luego la enmienda la iniciativa original

falta continuas actualizaciones creemos que es el camino a seguir actualizar y desde luego conocer cada vez mejor

que tiene en la población la tecnología define un nuevo marco de interacción social que es cambiante y que nos exige a todos poner en marcha nuevos

adecuación y adaptación a esa realidad cambiante y constante la tecnología

no es mala ni buena en ese ámbito general sino que es un instrumento que debemos aprender a utilizar ahí están en las nuevas tecnologías

con sus ventajas y con los riesgos que debemos ser capaces de identificar y esperemos que lo podamos ir haciendo aunque corre muy deprisa todo este mundo tecnológico todo este mundo de redes sociales y se impone desde luego

actuación seria y clara cuando la tecnología incide de manera tan directa en la educación de los niños y adolescentes nos exige redoblar entonces los esfuerzos para

orientación y ayuda que les permitan aprender a utilizarla con seguridad y esta responsabilidad corresponde sobre todo a los padres que en algunos casos pues no son del todo conscientes de la importancia de educar también en los entornos digitales

invierta en campañas de sensibilización en materiales para ayudar a hacer esa labor

la irrupción constante el avance de las nuevas tecnologías nosotros entendemos que la enmienda de los grupos que apoyan al gobierno ha recompuesto un poco la iniciativa

nosotros veíamos un determinado carácter interventor en organizar a las familias decir lo que pueden hacer o no hacer establecer lo que está bien y lo que está mal es decir hablaba de crear contenidos digitales etcétera vamos a ver

hablamos de otras cosas de otras formas de actuación no de crear contenidos digitales con carácter pedagógico

eso serán otras cuestiones las que haya que hacer por eso veíamos un poco de un exceso aunque sea y sería probablemente en la redacción

original en el sentido de la enmienda de totalidad que consideramos mucho más

y desde luego en el hecho de ver que no es una cuestión de crear contenidos digitales y que sea el gobierno vasco

ayudar a neutralizar a controlar a ver a conocer sobre todo cuál es el impacto de esas nuevas tecnologías nosotros veíamos que pretender que el departamento cree contenidos digitales pues no sé no iba a evitar

hay que hacer otro tipo de actuaciones otro tipo de cuestiones que nosotros vemos que

más definidos las características de las guías lo que tienen que contener esas guías

el perfil de niños y niñas y adolescentes y el perfil de padres y madres

que ser consumidores de contenidos digitales creados por el gobierno está claro

ya hemos visto que el primer punto de su moción inicial pedía al gobierno que realizase una evaluación bueno eso parece que ha desaparecido y un diagnóstico de las herramientas

utilizan los niños estamos viendo que ya hay numerosos estudios al respecto pero los niños entran básicamente en todo y los adolescentes y para ello no hace falta gastar dinero más que

toda la sociedad se conciencie sin ir más lejos se

de unicef que se ha citado repetidamente el análisis de la violencia contra la infancia y adolescencia

porque tenemos que decir una cosa bien clara y hay que hacerlo además en colaboración en colaboración con otras administraciones en colaboración con nuestro entorno con europa con el gobierno de españa

no se circunscribe a álava bizkaia y gipuzkoa es un problema global ni siquiera españa es un problema global los niños en euskadi

de manera diferente a los de otras regiones en estas cuestiones eso es un problema compartido y desde luego pues habrá que analizar todas esas experiencias y hacer las propias y actuar no solamente desde el ámbito

de la responsabilidad de la consejera artolazabal sino un ámbito global en este caso

es cierto señora gonzález tenemos el mismo objetivo creo que todos los que hemos participado aquí tenemos ese objetivo que es velar por la salud

pero no tenemos el mismo camino ni le damos la misma importancia a cómo realizar estas acciones

a los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno que dan más importancia

tiene en este aspecto nosotros desde nuestro grupo creemos que tiene que ser desde la educación desde el ámbito administrativo donde también se tiene

digamos que es un niño agarrado por las manos tanto por la familia como por la administración pues llega un momento en el cual muchas familias no tienen capacidad de educar a su hijo en el ámbito digital pues ellos mismos tampoco saben cómo comportarse en ese espacio

y tiene que ser desde en este caso desde la filosofía ya que estamos creando espíritus críticos

las guías ayudarán pero no llegarán a todos habrá un gran porcentaje de la población

en internet va a participar de las redes sociales como si no pasara nada y no es cierto

en el cual ya no se puede diferenciar lo que es real de lo que es mentira y la administración tiene que estar ahí

es ayudar a los jóvenes a pensar a pensar desde ese espíritu crítico analizar las situaciones y que tomen

si quieren exponerse o no quieren exponerse pero que sepan los riesgos que corren y los riesgos a futuro porque todo lo que pase en internet se va a quedar para siempre o sea la foto que vas a andar con trece catorce quince años

o cuando seas un cargo público como puede ser mi caso yo hasta hace poco podía tener una exposición mediática y ahora tengo otra pues todo eso

no lo conoce y hay que crear esa conciencia

de los niños en la calle creo que es muy parecida

también está la administración y tiene que recoger el testigo y hacer su parte

o menos a la educación familiar que a la educación escolar si he dicho algo es mi opinión personal pero creo

son la prueba que bien la formación académica o la ayuda que puedan administrar

son tan importantes como la educación familiar pero yo sí que creo que la responsabilidad primera es nuestra de padres madres tutores de los adultos

es algo complementario en la educación no en la formación académica pero bueno es mi punto de vista y creo que queda bastante claro la implicación del departamento de la consejera artolazabal pero de todo el gobierno vasco porque en mi primera intervención he dicho que están implicados en este tema el departamento de educación el de sanidad el de seguridad

creo que todos los departamentos colaboran mediante un trabajo conjunto y ahí se demuestra la implicación de este gobierno vasco eskerrik asko